para hacer frente a la pandemia y garantizar la educación presencial

de la administración educativa primero en la elaboración de los protocolos que nos están permitiendo garantizar la continuidad de la educación presencial en las aulas

agilizando la gestión propia para responder con agilidad a las necesidades que se nos han planteado así desde el comienzo de curso hemos contratado más de mil nuevos profesores y profesoras

hemos acordado un apoyo económico adicional a la red concertada para garantizar sus necesidades profesionales

contratos de sustitución para contar con todas y todos los profesionales necesarios cada día todos los días han sido cinco meses de entrega intenso trabajo y colaboración y hemos recorrido únicamente la mitad del camino

culminar el curso con la garantía de la educación presencial

ez daudela formula magikoak no hay fórmulas mágicas pero tampoco va a desaparecer esto y están ustedes consiguiendo normalizar y dar por buenos unos niveles de incidencia terribles

en qué índices hemos estado es como para respirar pero sabe usted que esos índices son

y sabe usted y le voy a recordar los datos del centro de prevención y control de enfermedades de europa que dice que cualquier tasa mayor de sesenta casos por cien mil habitantes en catorce días es alta

debe ser alarmante y a esto es a lo que tenemos que hacer frente y no veo que haya mimbres en ese plan reclama rigor para sí para poder darle la vuelta a esto sé que es difícil sé que tenemos muchas dificultades pero creo que hay cosas que se pueden

a los que nos tengamos que enfrentar si son mejores mucho mejor pero desde luego creo que este plan no puede responder al periodo de febrero

las dos cotas más altas se han producido el once de noviembre con ochocientos cuarenta y cuatro casos y el dos de febrero

ahora se ha reducido la incidencia por debajo de los cuatrocientos casos y creo que es un logro relevante teniendo en cuenta las circunstancias del mes de diciembre y principios de enero en un contexto de mayor movilidad y encuentro social y familiar

en el marco del labi y esta evolución a la baja responde por lo tanto a la previsión de la comisión técnica del labi y si seguimos cumpliendo las medidas con rigor

con el objetivo de llegar a los sesenta casos tantas veces mencionados por mí eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

zurea da hitza gracias señora presidenta señora vicelehendakari como sabe el próximo veintidós de febrero se van a cumplir diez años
desde que el gobierno de españa celebrara por primera vez el día de la igualdad salarial una fecha que nos sirve para sensibilizar en relación a la brecha salarial que sufren las mujeres con respecto

la necesidad de seguir concienciando en relación a esta grave discriminación que además se encuentra en la base de otras desigualdades que sufren las mujeres y va la unión europea a adoptar también esta celebración y lo cierto es que a partir de ese momento ha sufrido diferentes variaciones

con las diferentes políticas y actuaciones intensas que está desarrollando el gobierno en relación a la lucha contra las desigualdades y discriminaciones

el reto de seguir actuando contra la brecha salarial y promover la igualdad salarial en una estrategia además diseñada para fomentar el empleo decente y todos estos compromisos que usted ha adquirido además no son meras declaraciones en los presupuestos que se aprobaron la semana pasada en este mismo parlamento

para actuaciones concretas que están bajo el epígrafe de lucha contra la brecha salarial

y del talento y por cierto más del ochenta por ciento de esas medidas son medidas completamente

en relación a todo esto y además porque usted sabe del compromiso de los socialistas en la erradicación de todo tipo de desigualdades y el compromiso específico en la lucha contra la brecha salarial

ekimen berriekin pandemia ezin delako aitzakia izan berdintasunaren aldeko borrokan este veintidós de febrero además de tener presente al vicelehendakari y consejero fernando buesa impulsor de las políticas sociales recordaremos que la causa de la igualdad no estaba en las agendas de los gobiernos hasta hace diez años y nos permite recordar también que el trabajo contra la brecha salarial es más eficaz cuando desde el gobierno estabilidad política y una hoja de ruta clara para solucionar problemas estos días volvemos a ver en cataluña la dificultad para ofrecer esta gobernabilidad

los sentimientos y las identidades por encima de la salud el rescate económico y social y la igualdad en euskadi sin embargo estamos centrados en gobernar para todas y todos y esto es lo que nos permite también seguir el camino de la igualdad salarial no lo hemos olvidado ni siquiera por la pandemia

este aniversario nos llega además once días después de que este gobierno cuente con unos nuevos presupuestos que refuerzan nuestros programas e incorporan otros nuevos y gracias a esos presupuestos les informo de que estamos ya en el camino de impulsar nuevas acciones

en órganos de dirección de las empresas una manera de romper los techos de cristal

y desde lanbide diseñamos ya un programa de formación y contratación de mujeres en ámbitos masculinizados para el acceso femenino a trabajos donde están claramente subrepresentadas

también la próxima semana reeditamos el libro el trabajo de igual valor

los empleos sin sesgo de género van a contar todos los grupos con ese manual que haremos llegar también a los agentes sociales y económicos pero además les vamos a proponer a esos agentes que pongan en práctica esa guía en algunas empresas como proyecto piloto para sacar conclusiones de mejora y el próximo jueves celebraremos

además a lo largo del año publicaremos un estudio sobre el tratamiento de la igualdad

la inspección de trabajo se apoyará en la herramienta tecnológica de lucha contra el fraude laboral para realizar un plan específico

diseñaremos una nueva campaña que difunda el valor de los planes de igualdad planes que desde el ocho de marzo se extienden a empresas de más de cien trabajadores y por último en el próximo otoño

parlamentarios por tanto este aniversario no lo podremos conmemorar como nos gustaría pero nos hemos dotado de herramientas y presupuestos para que la pandemia no nos impida

y es que en euskadi según el último informe de la red nacional de vigilancia epidemiológica

datos tiene y de cada cien personas solo sabemos el ámbito de exposición de una docena de ellas es decir las cosas no se están haciendo bien en ese sentido

dudas los jueces si tenemos tan poca información es precisamente esta falta de información la que genera falta de seguridad jurídica y no

tener una ley anticovid pero la cuestión es para regular qué

se ha anunciado una ley anticovid se ha anunciado sobre todo como amenaza al no caso que nos pudiera hacer el gobierno de madrid pero no tenemos ni idea de en qué va a consistir esa ley esa ley en ningún caso va a permitir que puedan restringirse derechos o libertades por ejemplo sin una base científica técnica suficiente que lo

querría subrayar una cosa y es que se ha perdido aquí la ocasión

para aprobar la ley anticovid la ley anticovid mágica y perfecta pero de verdad eran los presupuestos vascos porque a través de los presupuestos es precisamente cómo se puede

y cómo se pueden tomar tantas y tantas medidas que sí son

no necesitamos una ley para aumentar las frecuencias del transporte público no necesitamos una ley para acompañar la decisión del cierre de la hostelería con medidas compensatorias ayudas económicas directas no echemos tanto la culpa a los jueces a la falta de leyes estatales asumamos que euskadi tiene mucho margen de maniobra todavía para actuar sin necesidad

para actuar contra el covid que

no me ha quedado nada claro en relación a lo que era su pregunta original y lo que ha sido su exposición

o de la sala de lo contencioso administrativo y veo que se alinea usted con el auto

cautelares ya se entrará al fondo de la cuestión

sobre los datos sobre lo que es también los criterios por los que adoptamos decisiones mire adoptamos decisiones atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias igual que otros gobiernos incluidos el español o los autonómicos en los que ustedes participan

hemos tenido que tomar decisiones para reducir el encuentro y la movilidad social el agrupamiento excesivo de personas en contextos de desinhibición en el cumplimiento de las normas y por tiempo también excesivo el veinte de diciembre respondía en irekia a preguntas de la ciudadanía y reitero hoy lo que

en la hostelería el problema es que los usuarios los usuarios relajamos las medidas de prevención en bares y restaurantes esto es lo peligroso la forma de ayudar a estos sectores es cumplir las medidas es la mejor forma de ayudar esto es lo que dije mire estamos actuando estamos actuando

articulamos un fondo covid planteamos los erte para el conjunto del estado tomando como referencia el modelo alemán

y fuimos nosotros quienes lo hemos planteado hemos aprobado dos decretos para complementar estas ayudas en la primera ola aprobamos programas por treinta coma siete millónes en noviembre aprobamos treinta coma cuatro millónes adicionales para la hostelería de las más de seis mil solicitudes de ayuda concedidas hasta ahora a la hostelería concretamente

el conjunto de la administración ha aportado medidas en favor de la hostelería así como de otros sectores no solo el gobierno las diputaciones forales

los ayuntamientos con aplazamientos de tasas ayudas directas o flexibilización de requisitos el nuevo presupuesto del gobierno vasco que ustedes votaron en contra el nuevo presupuesto del gobierno vasco que ustedes enmendaron a la totalidad

invito a que hagan una comparativa de las actuaciones compensatorias habidas en euskadi y en el resto del estado su tipificación su cuantía hasta el momento así como las previstas también para este año ha hecho usted alusión al auto de la semana pasada sí

formación y la importante labor de los expertos en la situación actual que padecemos

y el auto que dictó el juez no lo ha hecho además las resoluciones judiciales en el resto de los tribunales autonómicos que no voy a enumerar

a la conocida aquí comienzo por el final de esta pesadilla que nos está afectando que es

egun on lehendakari jaun andreok le pregunto hoy por la preocupación que suscita la improvisación y el desconcierto de su gobierno entre los ciudadanos un gobierno que se enfrenta cada día a una vía de agua sin cerrar las anteriores de sus departamentos medioambiente zaldibar es trescientos ochenta días después el mejor exponente de asignaturas pendientes han tenido tiempo de todo incluso

menos de asumir responsabilidades por cierto señora mendia

por no rectificar antes las presiones de su socio en empleo lanbide

indebidos y el colapso durante la pandemia en interior recuerdos del pasado y luego cae el señor ortuzar líder de su partido

pasando de los chicos de la gasolina que decía uno a los chicos del botellón

reconociendo la autoría organizada y señalando a bildu exigiéndole que pusiera fin a los ataques ante un tema tan grave pasaron ustedes en horas del agua al vino

son un gobierno sacudido a diario por un departamento de salud en el que es más difícil llevar la cuenta de las dimisiones que las estadísticas de la pandemia con un labi cuyos miembros un día nos sorprenden con vacunaciones nocturnas y al siguiente saltándose las normas para ir a jugar al golf un departamento de salud que nos tiene a la cola en la campaña de vacunaciones en toda españa una campaña que sindicatos y organizaciones profesionales tildan

caótica porque tanto te quejas tantas vacunas recibes

y la señora consejera sigue en su puesto pero sobre todo son ustedes

y que cuando pierde en los tribunales por decisiones mal fundamentadas pretende cambiar las reglas de juego a su conveniencia y ante los límites de la cogobernanza exige usted nuevos poderes para limitar derechos y también para esquivar controles judiciales y molestas justificaciones de sus decisiones eso y no otra cosa

cuando los tribunales cuestionan la legalidad de sus decisiones

por todo eso le pregunto cuándo se propone ponerse al timón de su gobierno

de improvisación permanente y políticas erráticas de su gobierno eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz emplea usted una metáfora marinera

podría decir que en nuestra situación como la de miles que participan en la lucha contra la pandemia

y a pesar del viento a pesar del oleaje y a pesar de las tormentas nuestro barco euskadi mantiene su rumbo tenemos una hoja de ruta una tripulación entregada y un timón firme y vamos a superar las embestidas de la tormenta y llevar este barco a buen

hace aguas por todos sitios y se lo digo usted si quiere no me haga caso a mí pero hágales a los sanitarios a los hosteleros vascos a tantos y a tantos otros sectores

cinco ejemplos de cinco departamentos suyos donde por ejemplo

los que hablan de vacunación caótica qué ha hecho usted con las vacunaciones irregulares se lo diré mantener en su puesto a quienes lo consintieron nos puede decir cuántos fallecidos hay en euskadi cuando antesdeayer mismo el número dos de sanidad decía que tenía estimaciones pero que no lo sabía

es euskadi españa la unión europea no puede salir a decir esas irresponsabilidades

esos hosteleros que van a pedir ahora indemnizaciones por su cierre obligatorio sin duda alguna son ustedes la mejor imitación del camarote

esta es mi ley y si no les vale hacemos otra ley ni división de poderes ni control jurisdiccional de su gobierno

horas rebajar expectativas otro lío en el que se han metido ustedes solos

porque en este barco la gran mayoría arrima el hombro y gestiona en la misma dirección

esta actitud a mí me resulta incomprensible egoera honi aurre egiteko

salud educación o protección social para garantizar la seguridad

con un fondo covid de quinientos cuarenta millónes de euros y un fondo de cuatrocientos treinta millónes para ayudar a las pequeñas y medianas empresas

pero cuando en ese mar proceloso ha tocado hablar de las demandas ciudadanas

no ha querido ni sentarse a la mesa de negociación del presupuesto ni sentarse

establece la estrategia de actuación hasta junio reitero mi mensaje a la ciudadanía cada día

mi preocupación y ocupación la mía y la de todo responsable político institucional en euskadi es buscar en cada decisión el mayor equilibrio posible entre la prioridad de garantizar la salud pública y el objetivo

no voy a hablar del auto de la sala de lo contencioso administrativo creo que es suficiente y de sobra analizar los autos en sentido contrario de los tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas y los pronunciamientos del propio juez si le digo que ante lo que curiosamente vivimos en euskadi en este ámbito sí pero porque vengo planteando la posibilidad de otra legislación de otra legislación desde la proclamación del estado de alarma desde entonces sí le digo que exploro las vías posibles para gestionar la situación

con garantías jurídicas llegando hasta el límite de nuestras competencias yo le invito señor iturgaiz a un cambio de actitud

a remar en la misma dirección que la mayoría de este país que la mayoría de este país esta crisis sanitaria emocional social y económica global y sin precedentes necesita también una oposición constructiva

apoya la autodeterminación me parece que son cifras incontestables en un contexto democrático los deseos de libertad de independencia de derecho a poder decidir libremente el futuro

ni el encarcelamiento de líderes políticos o el exilio ni multas millónarias ni montajes jurídico policiales han

en cataluña se han celebrado las elecciones sí y creo que es necesario hacer una lectura

de los resultados electorales empezando por la lectura o empezando la lectura por la formación que ha sido la que ha ganado la lista más votada

del pueblo catalán la sociedad se ha expresado de forma libre y democrática

he manifestado públicamente que espero que en esta nueva etapa se garantice la gobernabilidad y se garantice por lo tanto la estabilidad de las instituciones catalanas por el bien del pueblo catalán además es oportuno recordar que tanto el anterior govern de la generalitat una coalición de junts y de esquerra con el gobierno español

y de unidas podemos han apostado por reactivar la mesa de partidos entiendo por tanto que el amplio soporte recibido por estos cuatro partidos en las elecciones puede ser interpretado como un aval a la vía del diálogo y la negociación con voluntad de acuerdo en el marco de las instituciones

apelo siempre al principio de realidad internacional y social propia apelo también

y lo que representa como base para lo que pudiera ser una vía negociada bilateral

al respeto democrático de las decisiones legales que se adopten en el marco de diálogo político institucional bide horretan

señorías señora garamendi hace quince días le hice una interpelación que usted recordará sobre el tema del traspaso de la competencia o de los medios para el ejercicio de la competencia en prisiones

y creo que bastante compartida por todos menos por ustedes la cuestión en ese momento no me podía imaginar que

otra vez tendría que volver a interpelarla esta vez por una iniciativa señora garamendi de la que no conocemos

antipandemia o ley anticovid que de repente ha anunciado el señor lehendakari

eco también pues otros miembros del gobierno la ley antipandemia este es el motivo de esta interpelación qué es esto qué contenido va a tener

un miembro del partido que les apoyan en el gobierno el señor denis itxaso que es el

confusión qué es esta ley que no figura en el programa legislativo es otro globo sonda es no sé algún tipo de truco o de forma o de plan o programa o algo así no para ocultar la falta

como se ha dicho hoy aquí utilizando la metáfora o el símil de la navegación pues hace aguas ciertamente parece una cortina de humo

del estado de alarma generosamente además prorrogado mucho tiempo y que concede también generosas competencias a las comunidades autónomas cuyo presidente del gobierno es además la autoridad delegada en estas cuestiones a la hora de adoptar medidas en este tipo de cuestiones sabe usted o debe saber

y por otra parte la actividad también económica y social todo ello todo ello respetando una cuestión muy importante que es la proporcionalidad de las medidas que es el quid de la cuestión

en la famosa decisión ya que es una medida cautelar como además ha recordado también el lehendakari para garantizar

lo cierto es que en lo que llevamos de pandemia señora garamendi señores miembros del gobierno llevan ya tres o cuatro varapalos judiciales no tres varapalos judiciales gordos

a cada varapalo ustedes han respondido haciendo una nota de prensa declaraciones pues criticando que si los jueces que si se meten con los médicos que los expertos etcétera

lo que se ve es una falta de motivación de las decisiones que ustedes están adoptando no quiere decir los jueces no están diciendo que la decisión en sí misma

lo que están diciendo es que no está suficientemente motivada es que va

no me diga que no es que es falta de justificación mire en cualquier empresa privada en cualquier bufete es que ya no les contrataría nadie pero es que ya les habrían cesado vamos no se preocupe que no la van a cesar si no la han cesado a su compañera en sanidad pues no la van a cesar a usted es que cualquier empresa privada dejaría de contratarles en estas cuestiones aquí lo que subyace y antes también se ha comentado en otra pregunta es en el fondo un gobierno agotado

esencialmente son prácticamente las mismas personas que han ido cambiando de sitio han ampliado han reducido competencias y están refugiados en su mayoría absoluta

a través de los grupos que apoyan al gobierno pues para frenar a la oposición cuando hacemos propuestas cuando presentamos iniciativas la mayoría les puede servir efectivamente para tener

en la mesa del parlamento les puede servir pues yo qué sé para que nadie discuta a lo mejor preguntas sobre todo respuestas más bien breves cortas a veces cortantes incluso del gobierno

pero hombre no se puede ocultar que efectivamente tiene todos los elementos de lo que se conoce como un gobierno ya

insisto porque no responde a las necesidades no responde con suficiente frescura

a las necesidades que se están planteando analicemos la propuesta que se hace que es complicado analizar porque ciertamente no conocemos su contenido pero

hay una cuestión fundamental que están olvidando sistemáticamente que es la seguridad jurídica

de los hosteleros de los comerciantes de las personas de la sociedad en general la seguridad jurídica es un valor muy importante que tiene que ser defendido afecta a los derechos de las personas

y la respuesta que tienen ustedes siempre es criticar a los jueces en lugar de currárselo un poco más y presentar

pues oye presentar unos informes que sean sensatos y razonables el otro día le criticaba yo también un informe del gobierno

hay que aclarar qué contenido tiene que tener esta ley hay que aclarar cuál va a ser el contenido cuál va a ser el alcance qué es lo que pretenden hacer con esta ley esta ley antes decía el señor iturgaiz que parece la ley de la pataleta pero esta es la ley

y lo que quieren hacer es intentar digamos protegerla a través de una argucia procesal en este caso legislativa que sería

anulable por parte de un tribunal ordinario mire este no es tiempo de meros administradores

esto no es tiempo de gestores de administradores es tiempo de liderazgo es tiempo de gobierno de verdad tienen una visión muy patrimonialista de euskadi

en estas cuestiones pero con la pandemia se les están viendo ya las costuras y lo que es peor

hay muchos elementos que se han recordado aquí antes el caos de la vacunación el maltrato de los sectores más afectados por la pandemia

en el fondo esto muestra esto es un síntoma de agotamiento del gobierno es seriamente es algo serio es un síntoma de agotamiento del gobierno lo que falta es liderazgo

en lugar de efectivamente mejorar en este caso las medidas justificarlas dialogar con el sector proponerle también medidas alternativas al sector lo que están haciendo

oiga pues esto no es así es que no pueden hacer lo que les da la gana la mayoría absoluta es una cosa en sede parlamentaria pero es que afortunadamente vivimos en un estado de derecho es un recurso muy habitual de los gobiernos eh no solamente les pasa a ustedes cuando un gobierno tiene mayoría absoluta

o normas con rango de ley en este caso en el parlamento puede escaparse del control de las instituciones en un estado de derecho pero esto afortunadamente no es así por todo ello le pido sinceramente y además como suelo hacer que nos explique que nos aclare voy a escucharle con muchísima atención como este proyecto que se ha anunciado

hay muchos intereses en juego y una complejidad jurídica importante afectaría además a cuestiones económicas sociales y sobre todo afectaría a la vida diaria de las personas le pregunto hoy señora garamendi que es la consejera de gobernanza pública y autogobierno

cuáles son los propósitos de su gobierno especialmente en lo que se refiere al contenido y alcance de esta llamada ley vasca antipandemia que ha anunciado el señor lehendakari es decir

nos pueden explicar qué pretenden con esta ley muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza

tenkatu ditu eta ziurgabetasun handiko egoera bati aurre egin behar izan diogu al tiempo que la ciudadanía comenzaba a vivir esta nueva y desconocida realidad las instituciones públicas de todos los niveles

y previsiones para adaptarnos y dar respuesta a lo que estaba aconteciendo lo hemos dado todo durante estos largos meses para afrontar el gran reto que supone la pandemia

y de acción conjunta por parte de las distintas instituciones

fruto de ello son los planes bizi berri que han ido adaptándose a la evolución de la pandemia en euskadi

todas estas tensiones van dejando en evidencia algunas de las necesidades de mejora de gran parte de nuestro ordenamiento jurídico tanto estatal como vasco

si me lo permite de manera sucinta como si fueran los escalones de un edificio diseñado por el momento

la ley general de sanidad también del ochenta y seis ya nos ubicaba ante la posibilidad de que existiera un riesgo inminente y grave para la salud de las personas a su vez

que estimarán necesarias tales como la suspensión del ejercicio de actividades dicha ley diseñó un marco que atribuye indubitados mandamientos de intervención para encauzar las crisis de salud pública sin que las medidas adoptables

o grupos de personas determinables posteriormente la ley general de salud pública de dos mil once mantuvo el modelo de administraciones sanitarias

en lo que respecta a euskadi hace ya muchos años que diseñamos un marco de organización y de acción pública con nuestra ley ocho barra noventa y siete de ordenación sanitaria finalmente

de manera especial todo el nuevo mundo jurídico que abre el ya conocido real decreto de estado de alarma que es el marco que condiciona la actuación de todas las comunidades autónomas se trata de un marco con fuerza de ley estatal que obliga a todas las autoridades e instituciones del estado autonómico

de los pormenores que representan las convalidaciones en el parlamento español y sus vericuetos políticos condiciona en definitiva la forma de abordar la gestión pública en relación con los derechos fundamentales y las libertades públicas más allá de valoraciones sobre la oportunidad del momento político en madrid

para que las comunidades autónomas combatamos de la manera más eficiente posible la crisis de salud pública que padecemos el lehendakari

y le ha solicitado consensuar esos mecanismos legales para que cada comunidad autónoma pueda adoptar las medidas que considere oportunas para hacer frente a la expansión de la covid diecinueve con todas las garantías jurídicas es una prioridad para el gobierno vasco

instrumentos con garantías suficientes sería una vía sencilla proceder a actualizar el marco fijado por el estado de alarma cabe recordar además que la reivindicación de contar con todas las garantías jurídicas necesarias para adoptar aquellas medidas de nuestra competencia ha sido constante por parte del lehendakari del gobierno vasco a lo largo de toda la pandemia

dicho todo esto podemos llegar a comprender algunas de las incertidumbres y tesituras problemáticas en las que se encuentra la gestión pública de la salud en la coyuntura actual mientras tanto como gobierno

y a agotar todas las vías que consideramos a nuestro alcance sin pretensión alguna de eludir la labor de la justicia en el ejercicio democrático de sus funciones

consideramos que para concretar la genérica habilitación que ofreció el estado de alarma la autoridad máxima competente es el legislador vasco lo es en primer lugar desde la perspectiva de la competencia asumida en el estatuto de gernika

a la vista de la problemática y del alcance último que tienen las medidas que se adopten es una buena forma de involucrar y comprometer en la mayor medida posible

hemos iniciado una reflexión en torno a una nueva ley que podría aquilatar e incluso incrementar las garantías jurídicas de procedencia y efectividad

la evolución de los indicadores epidemiológicos conlleva un quehacer material de la administración que no puede estar sujeto a controversia jurídica de ningún tipo

a las decisiones de la autoridad sanitaria es necesario no generar inquietudes y al mismo tiempo transmitir la máxima certidumbre a la población y es que sin ánimo de polemizar ni de caer en la hipérbole

ni será la última en que oiremos que en la actual situación de crisis de salud la inseguridad jurídica tiene un coste en la salud pública una ley vasca

alguna clase de cobertura en torno a algunas futuras medidas para enfrentar la pandemia cuestión que estamos analizando

desde los servicios jurídicos del gobierno estamos acometiendo esta reflexión para dar a la sociedad vasca lo que es necesario en este momento el refuerzo en el proceso de toma de decisiones un nuevo régimen jurídico

sobre los mimbres con los que ya muy trabajosamente seguimos actuando pero sí

en definitiva se trata de exprimir al máximo nuestro ámbito competencial sin injerencia alguna en el espacio de los derechos fundamentales

siendo el poder legislativo el instrumento más potente con el que desde un plano jurídico están dotadas nuestras instituciones de autogobierno no podemos dejar de explorar todas las posibilidades para hacer frente a todos los retos presentes

que el autogobierno que no sé qué un poquito de autogobierno un poquito el estado de alarma un poquito que la situación es muy compleja un poquito que no sé qué

pues oiga no me deja muy tranquilo la verdad porque cuando se propone una ley en esta circunstancia tan compleja en eso puedo coincidir pues hombre

o si no se lo puede contar su servicio jurídico el mismo que pierde caso tras caso el constituyente cuando aprueba la constitución hace lo siguiente no establece al parlamento como la autoridad delegada para adoptar las medidas en sí mismas en un caso de estado de alarma

porque así se pueden controlar a través de la justicia ordinaria de manera relativamente expeditiva las medidas que se adopten esa es la esencia de lo que es el estado de alarma es verdad que vivimos en una situación compleja

más de lo habitual y más de lo que todos podíamos pensar todo eso es cierto y yo simpatizo con la postura que usted tiene que es muy complicada pero hombre yo creo que no se puede

con lo que eso va a suponer para la propia seguridad jurídica qué vamos a regular ahí derechos de carácter fundamental como usted dice usted bien sabe se ha leído la constitución

pero que pueden tener incluso incidencia estaríamos en lo mismo pero entonces para qué dice lo de la ley antipandemia para qué o sea para qué lo dicen

su respuesta me deja mucho más atónito y estupefacto de lo que ya estaba es habitual también en los gobiernos cuando quieren buscar una salida y hay un problema que les está acuciando el lanzar lo que se llama patada hacia adelante no es decir vamos a aprobar una ley

tenemos un problema con el clima vamos a aprobar una ley anti mal tiempo y ya está y con eso se arreglan los problemas con eso ya te quitas la presión mediática del momento difieres a un momento posterior la posible solución oye y ya el próximo que esté que arree pues mire esto es una cosa muy seria señora consejera y como la otra vez

me deja muy preocupado porque no me dice por dónde van a ir los tiros no me dice qué tipo de cuestiones pretenden regular me deja muy preocupado porque tampoco me dice qué periodo temporal pretenden abarcar me deja muy preocupado porque no me dice qué tipo de competencias

y me deja muy preocupado porque tiene toda la pinta de que lo único que pretenden con esto de sacar lo de la ley de la chistera es vamos a proteger

a unas medidas que tienen que ser adoptadas por el gobierno para impedir que el tribunal otra vez nos la eche para atrás

les va tirando medida tras medida y es que el profesor me tiene manía pues no señora garamendi no es que el profesor le tiene manía

aumentar la seguridad del procedimiento significa transmitir certezas y maximizar el beneficio de las medidas adoptadas mediante un mayor compromiso por parte de la ciudadanía

no nos podemos permitir desfallecer ahora es el momento de volver a dar un impulso

la población el lehendakari como autoridad delegada para la gestión de la pandemia y todo su gabinete nos vemos en algunos aspectos con las manos atadas ya lo ha adelantado la cogobernanza entre las comunidades autónomas y entre estas y el estado

siempre que sean respetados los ámbitos competenciales y sobre todo siempre y cuando contemos con las herramientas jurídicas necesarias para actuar con garantías

trataría de dotarnos de una mejor y más clara cobertura jurídica pero no alteraría las competencias entre euskadi y el estado por tanto el estado de alarma siendo nuestro marco insoslayable pero dentro de ese marco

que explore un mayor margen de intervención contribuya a generar certidumbres y claridad entre la ciudadanía

representadas en esta cámara demos una lección de compromiso a nuestra ciudadanía los servicios jurídicos del gobierno están valorando esta vía

y la viabilidad de esta ley vasca este texto normativo permitiría asegurar que en aquellas competencias que correspondan a euskadi el gobierno vasco

todas las medidas necesarias y contar con la máxima garantía posible indudablemente cualquier medida adoptada por este gobierno al amparo de la nueva ley

que ampare las decisiones que nos corresponda adoptar para hacer frente a la pandemia no está

relacionada con el auto más reciente de reapertura de la hostelería como ya se está malinterpretando estamos centrados en la lucha contra la pandemia y en dotarnos de todas las herramientas para acabar con la propagación de este terrible virus que lleva acompañándonos todo un largo año las medidas establecidas en el consejo asesor de plan de protección civil labi y el plan bizi berri tercero han de contar con un escudo que no las haga vulnerables porque son decisiones difíciles por supuesto incómodas impopulares en algunos casos pero tomadas con soporte científico y pensando siempre en salvar vidas estamos analizando

que permitiese concretar las condiciones para el ejercicio de determinados derechos que sin ser restringidos deben verse limitados para la salvaguarda de la salud pública

a reducir el riesgo que conllevan las diferentes expresiones e interpretaciones concretando medidas específicas y detallando las habilitaciones legales contenidas en el marco legal este es parte del análisis jurídico que estamos realizando ese detalle limitaría el margen del poder ejecutivo pero

podría evitar la necesidad de supervisión judicial así como la posibilidad de interpretaciones divergentes o ponderaciones contrapuestas del peso relativo de los intereses en juego

solmicro i hirurogeita zortzi ids ingenieria ese hogeita bat sec nextel panda security

de digitalización de las pymes euskal erkidegoak eskatua

a fin de disponer de un control total sobre el producto final bai eta hau ere gazteleraz irakurri dizuet

entender cuál es nuestro papel requiere que el papel de la administración pública también se asocie a los objetivos fijados por naciones unidas que dicen entre otras cosas que debemos responder a las demandas de la ciudadanía y a la creciente demanda de complejidad en el entorno global abordar una serie de temas sociales y económicos complejos como son la pobreza el desempleo la desigualdad y demás

nuestras políticas y habilidades para integrarlas de una manera eficaz en la economía mundial

descansa en las personas cómo no tanto como sujeto actuador como

de esas actualizaciones de digitalización pero existe un riesgo innegable que no vayamos a la velocidad adecuada y que no tengamos en cuenta a colectivos que se pueden quedar rezagados como consecuencia de la desigualdad y de la brecha digital

integra la disponibilidad universal de conectividad el acceso a dispositivos y a las capacidades digitales que se requieren en este momento y lo hemos visto durante la covid en los últimos años

a detallar todas las iniciativas del gobierno en su conjunto para que usted vea que en fin para no tener estrategia pues parece que algo tenemos pero bueno voy a empezar iniciativas orientadas a evitar la exclusión de colectivos en riesgo debido a que

para difundir experimentar estas tecnologías en el año pasado dos mil veinte se

la iniciativa betion del departamento de igualdad justicia y políticas sociales un modelo de atención integral a las personas mayores centrada

en definitiva más de nueve millónes de euros dedicados a este sector en el año dos mil veinte formación a desempleados para superar la transición digital ecológica del departamento de empleo lanbide

reciclanet donde ponemos a disposición de aquellos colectivos con menos recursos

eliburutegia del departamento de cultura un servicio de prestamo de libros digitales y recursos

en cuanto a iniciativas orientadas a evitar el retraso de la digitalización en las pymes

sailetik baita ere iniciativas orientadas a evitar el retraso de la digitalización de las micropymes y autónomos también parte del desarrollo que se realiza en el departamento el programa implantalariak lo hemos trasladado como un objetivo general a lo largo de este año el año pasado se utilizaron trescientos noventa mil euros

familiarizar mediante recursos de formación a microempresas y autónomos en las soluciones teic las más básicas las necesarias en cada una de las empresas

del departamento de turismo y comercio bueno pues dedicado a mejorar la presencia

las pequeñas tiendas de los comercios se han dedicado

iniciativas orientadas a apoyar la digitalización de pequeños ayuntamientos

políticos también desarrollado por el departamento que dirijo

parecido al barnetegi tecnológico dedicado a directivos de empresas pero en este caso a la parte política de los municipios de euskadi agendas de innovación local proyectos en colaboración también desarrollados por el departamento dentro de la agenda de innovación local con todos los ayuntamientos

máximas capacidades iniciativas orientadas a la generación de cohesión digital bueno

desde el departamento de gobernanza pública con las diputaciones forales

desde el departamento que dirijo por tanto en este momento estamos en unos niveles de acceso a banda ancha ultra rápida de los más elevados

iniciativas orientadas a activar y acelerar la participación de las personas en un entorno digital la iniciativa ikanos también del departamento

experto para definir y establecer las competencias digitales de cada una de las personas que puedan ser evaluadas certificadas y

pusieron en marcha doscientos mil euros prácticamente certificación de competencias digitales también con un certificado

que es un sistema de evaluación de competencias digitales que acreditan las capacidades que tenemos

referencia en cuanto a la participación de las mujeres hezkuntza sailetik eramaten dena eta

buenos días muchas gracias presidenta señorías

bien me gustaría que nos aportara datos señora consejera señora tapia y consideraciones sobre esa grave situación económica creada por un fracaso empresarial navarro que también nos afecta a nosotros y al gobierno vasco en particular y que ha causado pues un terremoto político en la comunidad de hermana la quiebra culpable de davalor salud

nos interesa señora consejera su valoración de cómo nos ha sacudido también a los vascos el aspecto económico del fiasco sabemos poco pero sí que sabemos que mediante sentencia del juzgado de lo mercantil de pamplona de veintiséis de marzo de dos mil veinte se calificó como culpable

al menos desde treinta y uno de diciembre de dos mil quince sin perjuicio de que en la sentencia se habla de

desde antes según dice la sentencia la quiebra y sus consecuencias económicas ha supuesto además la dimisión del consejero del gobierno navarro señor ayerdi y en esta debacle la

en cuyos órganos de gobierno y administración participa el gobierno vasco pues acumulan pérdidas de tres millónes trescientos diez mil ochenta coma treinta y cuatro euros

a la vista de esta grave situación solicitamos a la consejera respuesta

vasco conocen las relaciones comerciales de estas entidades y por ello cuáles son las razones que han llevado a estas empresas a acumular semejantes pérdidas en sus relaciones con el proyecto fallido
de la mercantil davalor salud sl muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko tapia andrea

me ha confundido su pregunta porque la ha hecho de dos maneras hace referencia a dos fundaciones y luego las llama empresas y yo sí quiero aclarar una cosa

con forma jurídica de fundación privada sin ánimo de lucro en la que el gobierno vasco es uno de los patronos de entre los treinta privados y donde

los han ejecutado la tecnología ha sido probada funciona se ha construido el aparato y la empresa contratante no abonó parte de esos contratos
esa es la situación eskerrik asko tapia andrea barrio jauna zurea da hitza sí fundaciones y una sociedad está bien claro

euros y es mucho dinero es decir señora consejera y usted tiene consejeros en esos patronos o en esos miembros en esos

interviene y está vinculado el gobierno vasco en ese sentido no o sea que davalor financiada con dinero del gobierno

con los informes desfavorables de los técnicos de sodena que eso también tendría que influir en determinadas relaciones económicas de las fundaciones y de la sociedad de tekniker

ese dinero y la situación fue la que es es decir primero un concurso de acreedores culposo y además un caos político en el gobierno foral de navarra el tribunal supremo abrió además una causa penal al señor ayerdi por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos

no obró bien y sí se pudo vincular también a esas fundaciones a

davalor hemos visto también a su señoría en reuniones con su homólogo navarro también

en relación con el tema que nos ocupa usted conoce muy bien esas sociedades

que esta cámara qué le cuentan los patronos los consejeros los representantes del gobierno en estas fundaciones qué le han ido contando durante estos años de fiasco empresarial es decir de tekniker de bikontes y de elkargi algo no ha funcionado vuelvo a decir son

que los técnicos de sodena además calificaban de desfavorable su situación financiera cuéntenos algo más por favor eskerrik asko barrio jauna tapia andrea zurea da hitza

probablemente estaría usted encantado en el parlamento navarro y le ha tocado estar en el vasco

esos proyectos se acuerdan entre los centros tecnológicos y las correspondientes empresas

en ninguno de los órganos de administración participan en esos contratos el patronato del que formamos parte aprueba el plan de gestión correspondiente al año siguiente y la cuenta de resultados del año anterior por tanto ahí es cuando conocemos la situación

ambos centros disponen de un cuadro de mando integral como el resto de los centros tecnológicos un plan de gestión una cuenta de resultados y unos objetivos que cumplir anualmente cada año

la mayoría tienen resultados positivos pero algunos tienen resultados negativos financieramente hablando

y puede ocurrir que una determinada empresa bueno por situaciones diversas no abone el contrato que se ha realizado sin embargo en este caso conocemos los impagos que se han producido en los centros tecnológicos por nuestra presencia en patronato

en ambas fundaciones estas pérdidas estos contratos no abonados han sido provisionados han sido las cuentas auditadas auditorias limpias y en este momento le puedo decir que en ninguno de los años ninguno de los centros ha dado resultados negativos en cuanto a elkargi en elkargi también formamos parte como uno

toma sus decisiones en función de un análisis de riesgos le tengo que decir algo más que si es verdad que da valor en un determinado momento se acerca como otras empresas

de euskadi para que tomemos la decisión o no de formar parte de esa sociedad se hace un análisis de riesgos y se decide no participar en esa empresa por tanto yo creo que las cuentas

clarificada en cuanto a la participación de euskadi en ese caso y nuestro conocimiento de que esa empresa se encontraba en concurso de acreedores es absolutamente indirecta nuestra participación directa como gobierno

momento único en el que se hace el análisis de participar o no en esa empresa desde capital riesgo insisto los centros tecnológicos cuentas auditadas

en situación complicada y que tienen problemas en el abono de contratos pero eso creo que ocurre

funciona y desde luego es una realidad eskerrik asko eskerrik asko

corresponde con una máquina cuya puesta en mercado se realiza mediante la emisión de una declaración de conformidad del fabricante

en tanto el fabricante termina sus pruebas es necesario que el complejo esté en servicio

que para evitar las emisiones que menciona estará funcionando con una temperatura de combustión garantizada por la combustión de gas natural suficientemente alta beraz

de gipuzkoa como el diputado de obras y medio ambiente josé ignacio asensio dijeron que sí que los hornos de la

entonces la cuestión es nos han estado mintiendo los mandatarios guipuzcoanos porque claro gurasos sí que denunció esta falta de verdad digamos y están siendo presionados bastante por la diputación foral y con amenazas de ser llevados a juicio es decir no es una cuestión menor además

dar la autorización ambiental integrada a la incineradora estoy hablando de la autorización ambiental integrada sabemos si se están emitiendo dioxinas la asociación anerreka solicitó información también

en la comisión del otro día se le remitió la información pero la verdad es que hay muchos días en los que no hay datos de emisiones es decir la información está

y esto denota cierta falta de transparencia

el artículo tres cuatro de la ley general de protección ambiental del país vasco fue anulada por el tribunal constitucional esta anulación fue promovida además por la diputación foral de gipuzkoa yendo en contra del autogobierno vasco de una ley nuestra

por qué era solamente para evitar la participación de gurasos en esta cuestión de la

claro nos dicen que no creemos alarma social pero lo que genera alarma social realmente son la falta de transparencia estas contradicciones entre instituciones vascas y todas que no existan datos de emisiones etcétera etcétera

los hornos al no ser unos aparatos que se fabrican en serie los hornos

la homologación de los hornos mejor dicho en este caso no es homologación la palabra sino la puesta en mercado y la declaración de conformidad ce unitaria es decir la europea se producirán cuando el organismo habilitado al efecto

a dichos hornos en el lugar de su efectiva instalación y funcionamiento y conocemos que el titular ghk

el cual continúa con el proceso de certificación la responsabilidad es exclusiva del titular y no es preceptivo ningún trámite adicional en la administración por tanto una vez que se finalice ese proceso que me consta que falta poco pues estará con el correspondiente no homologación insisto

desde luego en este momento las pruebas se están realizando a la temperatura necesaria para que las emisiones estén controladas y estamos

nada que ver con la autorización ambiental integrada la autorización ambiental integrada hace referencia a una serie de aspectos

y se le ha terminado de facilitar dicha autorización ambiental integrada la otra vez hablamos además de temas de energía de temas

con problemas en transformador pero por favor no mezclemos asuntos porque son realmente distintos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

señor consejero buenos días como usted sabe una de nuestras

es la defensa de todas aquellas familias vascas que quieren que sus hijos estudien en la lengua mayoritaria

pero muy importante y cuya respuesta nos va a dar una idea muy clara de cuál es su verdadera actitud

más allá de las palabras que hablan de consensos y de acuerdos considera usted que cualquier niño en euskadi tiene derecho a estudiar en el modelo a

pero detrás de la cual podremos ver toda su política de educación gracias eskerrik asko gil jauna erantzuteko

la respuesta a su pregunta es clara y está recogida en nuestra normativa

estableciendo entre las funciones que corresponden a este gobierno y cito textualmente y abro comillas la planificación de los modelos lingüísticos con el fin de hacer efectivo

así como el desarrollo de los mecanismos administrativos que garanticen

desde su aprobación hace veintiocho años este gobierno ha trabajado trabaja y trabajará para garantizar este derecho conforme

efectivamente creo que estos niños tienen derecho a estudiar

pero si realmente consideramos que eso es así entonces le insto a que ponga en marcha el modelo a en todos los colegios públicos de euskadi

en este curso no tienen oferta pública de modelo a en el noventa y dos coma cinco por ciento

de los municipios que no tienen colegio público ni los he contado

o en el noventa y siete coma tres por ciento de los municipios de gipuzkoa

por todos esos niños que sienten el euskera como una tortura que dificulta su aprendizaje que hay de todo

por esos profesores que aceptan con resignación esta política aunque no la compartan le animo a que trabaje efectivamente por garantizar ese derecho

y es un derecho que las familias ejercen de manera consciente y responsable y sabe usted qué eligen las familias

el modelo que consideran más adecuado para sus hijas e hijos ejercen su derecho a la elección y en la práctica eligen los modelos y b lo hacen de forma creciente y mayoritaria además cuando finalizan los estudios valoran positivamente estos modelos educativos hoy son más del noventa y cinco por ciento

y conocida esta realidad inapelable le propongo un cambio de actitud le propongo la conveniencia de adaptar su discurso a la voluntad y real de las familias vascas en lugar de seguir tratando de hacer ver

desde hace veintiocho años todas las evidencias pedagógicas y profesionales recomiendan estos modelos educativos las familias

las instituciones los avalan y este parlamento los apoya de forma mayoritaria yo diría que cuasi completa usted me ha hecho una pregunta y yo le he respondido y permítame que yo le haga otra pregunta no le parece que tenemos ya suficientes problemas como para buscarlos donde no los hay mi sugerencia es que se tomen en consideración

de más del noventa y cinco por ciento de las familias vascas y pasen a respaldar

que son más eficaces y ofrecen mejores resultados y sin duda nos permiten adaptar de manera responsable nuestra oferta educativa a las demandas

que pusimos en marcha en enero de dos mil diecinueve el programa está alineado con las necesidades y preocupaciones de la sociedad más joven y así se puso de manifiesto

ofrece ayudas mensuales durante tres años a jóvenes que además de cumplir otros requisitos

dependiendo del número de personas convivientes tal y como señala el informe recientemente publicado por el observatorio de vivienda

dice que en diciembre de dos mil veinte había mil seiscientos veinte ayudas activas pero en los dos primeros años del programa han sido

de estas ayudas a día de hoy y según datos aportados por la sociedad pública alokabide esta cifra se ha superado situándose los jóvenes a los que el departamento de vivienda ha ayudado a pagar el alquiler de su vivienda desde el nacimiento

hasta el momento hemos atendido toda la demanda que cumplía los requisitos para acceder a estas ayudas por tanto

que el programa está dando sin duda alguna resultados positivos eskerrik asko arriola jauna

badakigu zeintzuk gogoratuko ditugun mire no sé yo si últimamente

de buscar un piso en alquiler yo sí estoy en busca y captura de un piso concretamente

me paso demasiadas horas buscándolos me sangran los ojos porque veo

porque nos están timando y desde luego porque no existe ninguna alternativa porque desde luego este programa no supone ningún cambio en este aspecto porque es la guinda en el pedazo de pastelón que algunos se quieren repartir y el pastelón que nos están dejando a los jóvenes

nahi dut gaur nik hemen mire consejero ya le he dicho que estoy en busca y captura de un piso y tengo muchísima información al respecto vemos que para recibir la ayuda de gaztelagun no se puede alquilar

un piso de más de setecientos cincuenta euros y atentas porque les quiero hacer aquí un spoiler y es justamente que los pisos de setecientos cincuenta euros es que no existen

las bajas tasas de emancipación tienen su origen en problemas profundos y complejos que tienen que principalmente con la inestabilidad en el mercado laboral pero también efectivamente con la carestía y escasez de viviendas en alquiler

al igual que sus destinatarios es un programa que ha ajustado sus requisitos y su alcance en su primer año de vida porque si algo distingue y diferencia a nuestro departamento son los procesos de evaluación permanentes

las modificaciones introducidas en gaztelagun en requisitos de ingresos edad

en el dos mil veinte un incremento del ciento veintisiete por ciento y ello en una coyuntura especialmente difícil como es la situación que vivimos como consecuencia de la crisis provocada por la covid diecinueve y los datos que tenemos en este escaso mes y medio del año veintiuno ratifican esta tendencia

pero en estos dos años de vida se ha consolidado

del departamento de vivienda sino de todo el ejecutivo pasando a ser parte

ha venido para quedarse pero esta no es la única herramienta que estamos desarrollando para favorecer el acceso de la juventud a una vivienda asequible a las ayudas

al programa de alojamientos dotacionales a día de hoy tenemos

tenemos en proyecto de licitación trescientos cuarenta y uno y en estudio trescientos catorce total

y además estamos estableciendo cupos preferentes de hasta el cuarenta por ciento para jóvenes en la adjudicación de viviendas de alquiler pero

y estoy convencido de que cuando superemos la actual situación de crisis pandémica y podamos volver a una situación de mayor normalidad

de ser parlamentaria de esta cámara que me asiste y en ejercicio de mi labor de oposición con rigor y respeto que tengo que hacer

a la película de el padrino como sucedió ayer y dicho esto señora consejera voy a la pregunta usted anunció realizar una investigación exhaustiva en relación a las

y basurto una investigación de cuyos resultados no conocemos hasta la fecha estas irregularidades se produjeron el día tres y el día diecinueve y por eso le preguntamos para cuándo esta investigación y si esa

rigurosa y exhaustiva que llegue al fondo del asunto y que depure las responsabilidades que correspondan

por mucho que en cada una de sus intervenciones se empeñe en negar la evidencia es sabido conocido público que el departamento de salud ante

indagó interrogó y estudió lo ocurrido

unos hechos que nos parecieron inaceptables no tenían que ver con la denuncia sindical inicial fue el propio departamento quien hizo público lo ocurrido quien tomó medidas quien solicitó

a través de los grupos que sustentan al gobierno a dar cuenta

de la apertura de un expediente por un no registro de unas vacunas y del resultado de las indagaciones realizadas en otras organizaciones sanitarias integradas y seguimos atentos al desarrollo de la vacunación en osakidetza por cierto una vacunación

de vacunas porque se administran todas las que llegan generada la reserva para garantizar las segundas vacunas eskerrik asko

yo lo que hago es preguntar porque es mi deber como parlamentaria y espero que usted

es usted que parece que sí mire usted se comprometió en esta cámara

no los conocemos y nosotros vamos a exigir que ese expediente informativo llegue al fondo del asunto mire le decía que parece que la que ha faltado a la verdad es usted usted autorizó la vacunación

a todo el personal si usted sostiene que la señora collazos

por qué se vacuna si no es personal sanitario de primera línea

consiste en todo lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores me quiere responder por qué entonces de urgencias los médicos de urgencias de basurto que si son de primera línea se vacunaron el veintiuno de enero una fecha posterior a la de esta señora me quiere responder si el resto de profesionales que tienen la misma responsabilidad que esta señora del resto de las osi que ya se lo he preguntado tres veces me lo quiere responder ahora se vacunaron también el día quince

de una vez no a mí al conjunto de esta cámara y al conjunto de la ciudadanía vasca que es lo que se merece un gobierno que sea creíble y que diga la verdad

eso es lo que queremos señora consejera estamos en un momento absolutamente

de vacunación es que usted se tiene que ir por su incapacidad no tenemos plan hay un desorden absoluto no hay criterios

cuando no se ha acabado es que este gobierno está generando claramente desconfianza e incertidumbre en la sociedad vasca y en un momento tan delicado certezas necesitamos confianza y lo mejor para recuperar esa confianza que en este momento necesitamos la ciudadanía vasca

es que un gobierno gestione adecuadamente una crisis como la que tenemos encima de la mesa y usted pues

no está dando la talla y por eso creemos que lo más conveniente para recuperar la credibilidad

es que se produzca ya de una vez por todas un relevo en el departamento de sanidad señora consejera eso es lo que pedimos

ni este gobierno ni esta consejera han faltado ni faltan a la verdad

muy claro si usted no quiere escuchar la verdad ese es otro problema pero ni el gobierno ni esta consejera han faltado a la verdad ya veo que usted aprovecha cualquier ocasión para meter otro mensaje no el de la verdad mire

los principios y criterios de vacunación el orden de preferencia

son más que conocidos es imposible desconocerlos porque habiendo tantos agentes implicados en su diseño tantos representantes públicos y privados

cualquier novedad sobre los mismos antes de que lleguen allí

y euskadi está siguiendo esos criterios le recuerdo que esos criterios no son leyes

y por ahora escasas y se basan en tres principios el de necesidad las vacunas son un recurso esencial

el de equidad hay que tener en cuenta las vulnerabilidades desigualdades riesgos y necesidades de los grupos el de reciprocidad exige proteger especialmente a quienes soportan importantes riesgos

los servicios de prevención han determinado qué personas en qué puestos y en qué funciones son prioritarios por su exposición a la covid esi ha sido para nosotros lo más prioritario y lo que ocupa nuestra atención cada día pero el cese

no se han producido porque esos criterios nos hayan seguido correctamente

los criterios éticos que inspiran los criterios de vacunación no les tocaba y recibieron unas vacunas que hacían más falta a unas personas más vulnerables o expuestas y esa es la verdad

del club de malasmadres presentó su estudio esta semana en el que se ve que casi una

el veintidós por ciento ha renunciado a todo o parte de su trabajo durante el último año para cuidar a sus hijos e hijas de este veintidós por ciento de mujeres madres que ha renunciado a todo o a parte de su trabajo un veintiuno por ciento ha cogido excedencias o días sin sueldo

al cien por ciento sin sueldo también y un setenta y cuatro por ciento ha tirado de sus días de vacaciones para atender a los menores durante las cuarentenas preventivas

egingo bagenio daukan ondorio guztiekin y de estos datos se deduce que son las madres las que están costeando con sus sueldos con su tiempo las cuarentenas preventivas de los niños y niñas en el plazo de un año lo que detectamos es que el coste de la pandemia lo están sufragando ellas

o cogiendo días y excedencias sin sueldo o incluso vacaciones con tal de no dejar a los niños y niñas

hacia un sistema automatizado para su concesión e

se resolverían así muchos de los problemas relacionados con la gestión

eta aurrerago kortajarenak berak pleno honetara eztabaida ekarri genuenean esan genuen bezala se planteaba entonces que las ayudas que diseñáis se abonan meses después

lo que supone que las familias tienen que mantenerse sin ingresos durante el tiempo

la excedencia o la reducción de jornada más el tiempo que tarde el gobierno en resolver

algo que hace imposible que las familias más vulnerables que las familias sin ahorros

eran y son cada vez más según los últimos datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales antes de la pandemia puedan acceder a estas ayudas qué decir de las familias encabezadas por una mujer algo que llamaba poderosamente la atención sobre todo teniendo en cuenta que las ayudas buscaban proteger especialmente a los colectivos más vulnerables y no han podido

si no son embolsadas en el momento mismo de la petición ya que no podrán hacer frente a la situación sin esa ayuda beharrak orain

y el no querer modificar las formas de pago pese a que este es un problema

que ya lo señaló el ararteko como he venido diciendo y que viene como señalaba anteriormente incluso recogido en el diagnóstico del último plan de apoyo

más vulnerables que por mucho que lo planteéis en los programas que planteéis en estos momentos no va a ser una realidad para ellas porque la conciliación no es cosa de pobres que para conciliar hay que tener dinero

no casa si es cierta esa intención que se repite tantas veces de no querer dejar a nadie atrás eta balorazio bat eskatu nahiko genizuke alarma egoera

en la vida cotidiana se materializa que los cuidados en nuestra sociedad

nos encontramos ante el gran reto de reestructurar las relaciones laborales familiares sociales e institucionales en el que se resuelve el cuidado

para construir un nuevo escenario donde los cuidados y la conciliación sean asumidos como una cuestión central el reto es que se trabaje para que todas las personas

y que este derecho se ejerza atendiendo criterios de justicia social y de género

desde el gobierno vasco trabajamos de manera transversal para impulsar una reorganización social de los cuidados que entre otros objetivos permita un reparto equilibrado de los mismos las medidas que desarrollamos en materia de conciliación atienden también a este objetivo transversal

ese amplio marco integra todo lo que hemos vivido en los últimos meses todos los aquí presentes

a nuestros seres queridos todos tenemos alrededor gente que lo ha pasado mal en esta pandemia somos conscientes del dolor con el que se ha vivido

también nos ha tocado ver cómo el cierre de las escuelas o los centros sociales que en un principio iba a ser para un par de semanas se alargaba semana a semana generando

de la noche a la mañana las familias han tenido que convertir los hogares en centros escolares en centros de trabajo o en espacios para el ocio una situación totalmente excepcional y que su evolución iba cambiando día a día

ir tomando decisiones que sirvieran para dar respuesta a las nuevas necesidades de las familias y sirvieran para paliar la preocupación cada vez más creciente de las familias

durante la evolución de la pandemia usted ya las conoce de sobra incluso he de trasladarle que comparto

para eso destinamos más de setenta millónes de euros anuales en políticas de apoyo a las familias claro que las familias monoparentales requieren un apoyo especial queremos proteger y dar oportunidades a todas las familias a todo tipo de familias

por eso en la última modificación del decreto del año dos mil diecinueve ya se ampliaban las semanas de disfrute de los permisos por nacimiento

y venimos adecuando las políticas a las necesidades señora etxebarrieta claro que las familias numerosas requieren un apoyo adicional por eso se incrementaron también las ayudas a estas familias las familias que cuentan con un miembro en situación de dependencia y cuidan de ellas también tienen una consideración especial y se les incrementan las ayudas en este decreto y lo mismo pasa con las mujeres con hijos a cargo que han sufrido violencia machista retoman una nueva vida

se les incrementa la cuantía a recibir claro que hay que apoyar a las familias más vulnerables y en ello estamos señora etxebarrieta como le decía comparto con usted el análisis de que es necesario equilibrar las cargas de tareas domésticas y de cuidado

su parte en estas tareas creo que todas y todos aquí presentes compartimos esta afirmación y por supuesto que definimos medidas

más en las tareas de cuidado es por eso que pusimos en marcha de manera pionera las ayudas para la equiparación de permisos por nacimiento es fundamental que los hombres se acojan a las reducciones de jornada o de excedencias

durante más tiempo porque también hubo experiencias que se les daba más dinero pero que no fueron

me pregunta usted por corregir disfunciones y creo que le estoy dando ejemplos prácticos y reales todos ellos de manera ordinaria y en esa labor de mejora continua de las políticas que desarrollamos

actuamos de manera rápida flexibilizando las ayudas dotando de más recursos las partidas de conciliación además de duplicar las cuantías concedidas es verdad que no tuvimos el éxito que nosotros pensábamos pero eso no significa que nuestra voluntad

en este ejercicio de flexibilización se modificaron también las condiciones eliminando la limitación del periodo mínimo subvencionable de cincuenta y nueve días

cuarenta y uno millónes para la conciliación pueden ser insuficientes como casi todo en la vida y en cualquier presupuesto

muy importante es una inversión relevante y estamos constantemente analizando

la convocatoria a la que usted hace mención dotada de cuatro millónes de euros

la aprobación del presupuesto nos va a permitir poner en marcha nuevas ayudas esta ayuda estaba dotada con cuatrocientos mil euros el año pasado debido

su cuantía y es lo que hemos hecho por cierto que ustedes no presentaron ninguna enmienda a los presupuestos en materia de conciliación desde las asociaciones de familia se solicitó al departamento la flexibilización durante este curso escolar de las ayudas a la contratación de personas trabajadoras

y gracias a estas nuevas ayudas se posibilita que padres y madres con hijos e hijas a cargo puedan seguir desarrollando sus trabajos y sus carreras profesionales y principalmente somos beneficiarias las mujeres de estas ayudas con estas ayudas se pretende superar al menos

y con estas ayudas avanzamos en el reconocimiento social y económico del trabajo doméstico y de cuidados realizado dentro de los hogares

estas ayudas van a permitir a las familias con hijos e hijas de cero a catorce años que puedan acogerse

del contrato que realicen con el refuerzo y la mejora de estas líneas de ayudas contribuimos como le decía a que las mujeres no tengan que elegir entre el cuidado y el desarrollo profesional

mujeres que ven condicionados sus ingresos en el presente pero también en el futuro como consecuencia

la conciliación de la vida laboral y familiar es un problema común en todas las sociedades europeas y occidentales de los agentes sociales y también de la administración vasca

somos conscientes que ante situaciones excepcionales es difícil acertar a la primera

de apoyo dos mil dieciocho dos mil veintidós a las familias con hijos e hijas que trata precisamente de dar una respuesta a esta necesidad

ya hemos ido corrigiendo disfunciones aumentando los recursos y especialmente en el ámbito de la conciliación creo que hemos compartido preocupaciones su grupo y el mío y creo que tenemos incluso algunas soluciones comunes
para poder avanzar en una corresponsabilidad y en una igualdad real mila esker eskerrik asko artolazabal andrea

horretan bakarrik zentratuko dut huts egin duzue y estaba hablando exclusivamente del pago por adelantado

desde una perspectiva ya no solo de las mujeres sino desde una perspectiva de clase que las personas que tienen problemas económicos que están en el umbral de la pobreza que también concilian que también tienen hijos e hijas que también necesitan de estas ayudas

podrán acceder a esa prestación porque nunca van a poder contratar previamente es que es tan simple como eso

porque el sesgo de género evidentemente va a tener que ser enfrentado desde diferentes ángulos y hoy no nos vamos a meter en eso pero

teniendo en cuenta que el covid ha agravado la situación económica de los que ya lo estaban pasando peor que son familias monomarentales la mayoría de ellas mujeres víctimas de violencia machista usted muy bien ha identificado cuáles son ese amplio colectivo tan heterogéneo pero tan amplio a nuestro pesar

adelantado nunca nunca van a poder contratar a una persona porque no van a tener

para poder esperar a que se les conceda esa ayuda por eso estamos hablando del pago por adelantado y el departamento de vivienda en las ayudas extraordinarias que establecieron

sí que pudieron y sí que incluyeron este pago por adelantado de eso le estamos hablando ustedes jarraitu ahalko duzue

zabalgarria izango dela el covid reduce en gipuzkoa la demanda de cuidadores cuidadoras a domicilio y eleva la carga familiar es que

la petición por parte de las familias porque no pueden acceder a contratar a una persona y nos parece estupendo

la situación de las trabajadoras del hogar que se saque del ámbito sumergido este empleo pero de nuevo

en esa manera de resolver de hacer malabares con la vida que tengan con la vida privada de cada una o la carga

o se elevará el trabajo sumergido también porque muchas mujeres trabajadoras del hogar que tenían contrato han pasado de nuevo

no le voy a llamar así al ámbito sumergido porque las familias no pueden afrontar lo que supone el gasto

yo estoy dispuesta a revisar todo lo que haga falta para poder mejorar las prestaciones y los servicios que desde el gobierno podamos ofrecer a todas las familias

estandarizada es muy compleja a mí también me supone a la hora de la gestión

una reflexión en cuanto a los requisitos que nosotros solicitamos para poder ser beneficiarios de las ayudas que

porque sí que es verdad que cuando hacemos esas evaluaciones en función de los resultados bueno pues

familias que queremos llegar aun teniendo los recursos por lo tanto en algo no estamos haciendo bien las cosas y desde luego señora etxebarrieta yo siempre le he dicho que no tengo ningún problema en reconocer los aciertos y también los fallos y si tenemos que mejorar lo vamos a hacer y es algo que internamente en el departamento tenemos claro que tenemos que analizar

nos preocupa la situación de las familias como usted también ha expresado

antes de la pandemia estábamos buscando las fórmulas más adecuadas para poder

de todas estas ayudas porque a veces no solo es cuestión de dinero sino es cuestión de cómo gestionamos estas ayudas para que podamos llegar a todas las personas que la necesitan

de la gestión de la misma nos llevaron a tomar medidas urgentes en un principio y adaptar y flexibilizar en un segundo momento nuestras ayudas

dar una respuesta urgente a una situación muy compleja inicialmente no sabíamos cuáles iban a ser esas

adecuar lo que ya teníamos previsto porque como usted sabe también la tramitación en este gobierno y en esta institución es complicada y queríamos

necesidad concreta y además que esa necesidad estaba ya trabajada con las asociaciones estaba compartida y sabíamos qué es

en el que hasta el año dos mil veintidós tenemos las líneas de actuación y también creo que

objetivos para avanzar y reorganizar el tema de los cuidados y en esa dirección están encaminadas todas las acciones que el gobierno hace no solo desde el departamento de igualdad justicia y políticas sociales sino también desde otros departamentos nosotros fuimos pioneros a la hora de equiparar los permisos parentales iguales e intransferibles se ha hecho una apuesta

se está trabajando en la estrategia del plan de acción contra la brecha salarial hoy mismo en este pleno hemos hablado de ello por tanto la próxima aprobación de la modificación de la ley de igualdad

en cuenta ese trabajo doméstico ese ámbito de los cuidados y que puede ser también una herramienta para poder avanzar la futura ley de igualdad que se aprobará en este parlamento

para situar el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro también el proyecto de ley recoge y desarrolla el concepto de conciliación

para hacer hincapié en que esto debe ser en todo caso una conciliación basada

que con la colaboración de los grupos de esta cámara la aprobación de esa ley contribuirá a seguir dando pasos en la dirección correcta y sinceramente señora etxebarrieta yo creo que nos podemos encontrar sus planteamientos no están muy lejos de los nuestros y es que además

aparecen iniciativas que nosotros también hemos recogido en esa modificación de decreto y en este presupuesto

atención y cuidado respecto de hijas e hijos menores de dieciséis años nosotros lo hemos ampliado hasta los catorce porque entendemos que un joven con dieciséis años puede ya tener

ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos e hijas menores eso es lo que hemos hecho con esta ampliación de ayudas antes era cero tres ahora es

de verdad señora etxebarrieta creo que tenemos un camino en el que podemos encontrarnos y podemos avanzar

y nos hemos dotado ya de herramientas que no son suficientes y que tenemos que seguir avanzando pero creo que el esfuerzo que hace este gobierno es importante

madre monomarental de un niño de cinco a turnos en una fábrica mil cuatrocientos euros al mes le llega lo justo

las ayudas que publicitan desde su departamento no son para ella jon ana dos hijas custodia compartida trabajan hoy sí y mañana no autónomas del sector cultural o comen sus hijas o no come nadie cuatro confinamientos encajes desencuentros bien difícil conciliar las ayudas que anuncian no son para ellas

tampoco le va a llegar esta ayuda considera de verdad que la nueva línea de ayudas es suficiente para la mejora de la conciliación

de todos los modelos familiares presentes en nuestra sociedad benetan uste duzu horrek berdintasuna sustatzen duela eskerrik asko

señora gonzález como bien dice la interpelación que la señora etxebarrieta me ha realizado va en los mismos términos en los ustedes también me preguntan

le he dejado claro que estamos comprometidos con las familias vascas he intentado ser clara a la hora de explicar cuáles son las iniciativas que nosotros hemos puesto en marcha me temo

hace ya algo más de once meses cuando la pandemia empezó a dejar sus primeros efectos en forma de cierre de centros escolares en euskadi recurrimos a las ayudas de conciliación y también las reforzamos y las flexibilizamos desde el primer cierre que ocurrió en labastida como creo que todos ustedes recordarán incluso antes de la declaración del estado de alarma pusimos en marcha

en las primeras semanas de confinamiento y ante el cierre de centros escolares y los centros de mayores también tomamos otra serie de medidas de forma

aplicamos una nueva línea y sobre todo flexibilizamos y extendimos las ayudas que ya existían en materia de conciliación porque teníamos que tomar decisiones rápidas y urgentes y era urgente aplicar estas nuevas medidas y por eso tomamos esas decisiones para actuar con celeridad gogorarazi nahi dut laguntza horiek eta bi

estas ayudas han llegado a mucha gente durante muchos años y ha beneficiado a muchas familias

tienen más de dos décadas de vigencia y que además se han ido mejorando y se han ido flexibilizando son años de experiencia de errores también de aciertos que nos han llevado a amoldar las líneas de ayuda que lanzamos y como usted indica

para la contratación de personas cuidadoras que creemos que es importante y que además también responde a las necesidades mostradas por las asociaciones de familias

de cero a catorce años y van a poder solicitarlas desde el uno de enero

asociándolos al curso escolar y además tienen vocación de quedarse

para este fin casi cuatro millónes de euros sinceramente señora gonzález no sé si nos vamos a poner de acuerdo si es suficiente o no pero sí lo que quiero trasladarle es que nuestra prioridad es ayudar a todas las familias vascas en las necesidades con las que se encuentran en su día a día y para nosotros la conciliación es una de ellas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

supongo que ni a ainhoa ni a jon ni a ana ni a oihana ni a alguna de las que estamos aquí sentadas porque para nosotras esto es poner un parche

es un derecho y se vende desde el gobierno como que es un privilegio al que se accede si demostramos que no desatendemos el trabajo productivo

y además creo que lo hacen de una forma patriarcal y economicista porque dónde están las políticas de apoyo a la diversidad familiar

nosotras siempre hemos apoyado las políticas que refuercen y faciliten la conciliación pero hay que partir de diagnósticos certeros y ustedes tienen un montón de diagnósticos

uno que no se puede ignorar la base socioeconómica de la que partimos dos que no se puede ignorar que nuestra tasa de empleabilidad y ocupacional es distinta a la de los hombres ni siquiera la carga de cuidados que asumimos

nos venden este tipo de ayudas que no tienen a ninguno de esos factores y que incluso corren el riesgo de potenciar brechas que dicen querer reducir no se han explorado ni vías como el teletrabajo con perspectiva feminista ni la política más efectiva de empresas con la conciliación o por qué no se apuesta por el servicio público de cuidados bueno ya nos dijeron en septiembre que no les interesaba

para necesidades nuevas en serio vamos a seguir usando criterios que cuando no existía una pandemia el cuidado es un derecho que debería garantizarse y sigue supeditado a las condiciones del mercado laboral pero nada

pretenden dignificar el cuidado con el peor de los contratos que hay en el mercado laboral con el peor valorado que así lo denuncian las trabajadoras del hogar por qué siguen poniendo ese contrato como marco de referencia bueno

y así además perpetuamos las cadenas globales de cuidados emakume guztien

artolazabal andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea nuestro objetivo siempre es analizar la realidad y evaluar las políticas
para poder atender a las necesidades de la ciudadanía vasca y además hacerlo con objetividad

mikrofonoa itzalita hitz egin du y acertando en lo que ponemos en marcha lo he comentado anteriormente

son unas ayudas para todas las familias para todas las familias que necesiten este tipo de ayudas para poder conciliar nosotros yo no voy a entrar ni en el patriarcado ni el feminismo

las políticas que el gobierno y que el departamento pone en marcha tenemos en cuenta todas las realidades de todas las familias de este país la diversidad

en la anterior intervención hablábamos de monomarentales hablábamos

creo que además la propuesta que hacemos es una propuesta que intenta ofrecer ayudas y también evitar ese trabajo

y a todos señorías señores consejero señora consejera

el pasado veintiséis de noviembre se aprueba definitivamente en sesión plenaria del ayuntamiento de bilbao el plan especial del museo de bellas artes para ampliar el edificio actual con el proyecto de norman foster y el estudio local

bien el debate en relación con las infraestructuras culturales de bilbao parece que está servido de nuevo y ello también de la ley de patrimonio cultural vasco que el parlamento aprobó en dos mil diecinueve esa ley

una de las leyes importantes de la pasada legislatura la ampliación del museo de bellas artes de bilbao por cierto magnífica pinacoteca de arte clásico de arte contemporáneo que a todos nos permanentemente con sus exposiciones ha levantado la tapa

sectores más bien vinculados también a la defensa del patrimonio cultural en bilbao o a la arquitectura

parece ser a una intervención más allá de una simple reforma en relación con las características que algunos

hay un debate también entre informes de diferentes instituciones o de encargos

el historiador azpeitia y el arquitecto cámara que ha sido asumido

con lo procedente del proyecto y también el recientemente del que hemos tenido noticia y del que se ha tenido noticia el elaborado por la comisión de monumentos de la real academia de bellas artes de san fernando que dice que el proyecto de foster y uriarte no respeta la ley de patrimonio ahí está la polémica una cosa que es muy importante y que todos queremos que tenga el mejor de los futuros posibles que es el museo de bellas artes de bilbao y su entorno y sobre todo pues también ya que estamos en el parlamento el respeto a la legalidad vigente que nosotros mismos hemos aprobado parece ser que

proyecto agravitas que es el proyecto de foster y de uriarte pues define que la propuesta es una estructura

sobre las construcciones que se realizaron primera inicial en mil novecientos cuarenta y cinco y luego las reformas o ampliaciones de mil novecientos setenta o dos mil uno

la real academia de bellas artes de san fernando el proyecto quebranta varios puntos del artículo treinta y cuatro de la ley de patrimonio cultural vasco eso

dirección de patrimonio su departamento tendrá algo que decir porque esta entidad la academia de bellas artes pues ha dicho que entienden que el proyecto quebranta el artículo treinta y cuatro de la ley de patrimonio cultural vasco que decreta como intervenir en un bien protegido sin perjudicarlo

conjunto eso dice y el informe señala la lesión también del artículo cuarenta y nueve

sobre la prohibición de elementos que originen contaminación visual

entonces la comisión de bellas artes de la academia de san fernando dice que está hablando

apropiado hablar de una cacofonía que de armonía en relación con la ampliación bueno esto desde luego se contrapone al informe que azkarate azpeitia y cámara han presentado en relación con la cuestión o sea que hay un debate también

academia de bellas artes que ha recibido el ayuntamiento de bilbao también el departamento de cultura según informaciones

indica que ninguno de estos principios básicos se tiene en cuenta

que pretende además en relación con esa reforma triplicar con quince metros añadidos

la altura del edificio y además hablan de invadir el parque de doña casilda que está ahí en donde está ubicado el museo

los académicos que el ayuntamiento no haya exigido al proyecto ganador del concurso cumplir con la normativa del plan general de ordenación

el edificio a la ciudad es la ciudad consolidada la que dicen se acopla al edificio

principio urbanístico no está bien claro que bueno queremos saber la opinión

sobre este informe y sobre esta polémica que existe en relación con algo que está participado por el gobierno vasco donde tendrá que emplear en relación con estas cuestiones de su ampliación y donde lo que se tiene es que cumplir

polémica bueno de momento parece ser que es una polémica pues muy instalada

en lo patrimonial en lo técnico no hemos visto también incluso

ciudadana con algún manifiesto que está ahí y que está funcionando en relación con la

vulneración de esas leyes y lo que queremos es desde luego interpelar y saber del consejero que tiene que ser

cuáles son los propósitos del departamento a la vista de esta situación creada en relación con la definitiva ampliación del museo de bellas artes de bilbao que vuelvo a decir es un lugar y una pinacoteca singular

queremos que conocemos y que admiramos en cualquier caso también como parlamentarios tenemos que saber si ese artículo treinta y cuatro de la ley de patrimonio cultural vasco de dos mil diecinueve

en sus puntos cuatro cinco siete o ese artículo cuarenta y nueve de entorno de bienes culturales en su apartado uno o ese artículo cincuenta

en su párrafo también uno apelados por la comisión de monumentos de la real academia

de bellas artes de san fernando se vulneran no es decir ese es el elemento fundamental es un una cuestión que puede tener una valoración

estético o de oportunidad pero lo que nos preocupa es el debate jurídico no el debate de cumplimiento de las leyes y en ese sentido señor consejero

egun on guztioi gracias por traer a esta cámara el debate sobre la ampliación del museo de bellas artes de bilbao es uno de los proyectos culturales más importantes que se va a desarrollar en euskadi en esta legislatura y creo que es importante que sea objeto de análisis y debate

solo lamento que el motivo por el que me interpela sea consecuencia de la enésima polémica que se plantea en euskadi en torno a las infraestructuras culturales y el cuidado del patrimonio es evidente que el tema tiene su complejidad no hay más que recordar el debate que vivimos en la década de los noventa con el proyecto de construcción del museo guggenheim en bilbao

al museo de bellas artes bienvenido sea el debate siempre que transcurra en términos razonables y objetivos y resulte instructivo y constructivo el gobierno vasco ha participado desde el primer día a través de nuestro departamento

y toma de decisiones que se ha desarrollado en torno al proyecto de ampliación del museo de bellas artes de bilbao lo hemos hecho en primer lugar porque la ampliación nos parece

necesaria estamos convencidos de que la cultura es uno de los ámbitos que entre otras actividades puede ayudar a este país a ser conocido y reconocido en europa y las artes plásticas y visuales son una de las expresiones de actividad cultural que mayor potencial tienen para

por la importancia de su colección así como por su capacidad de desarrollo crecimiento y consolidación puede ser una palanca importante para ello desde esa convicción hemos participado junto al equipo del museo la diputación foral de bizkaia el ayuntamiento de bilbao y los miembros del patronato de la fundación en la reflexión y aprobación de plan estratégico del que deriva el proyecto de ampliación

reitero estratégica hemos participado tanto en la convocatoria del concurso de arquitectura como en la elección del jurado independiente y profesional

una de entre las ideas presentadas el concurso se caracterizó por el elevado nivel artístico conceptual y arquitectónico de las propuestas cincuenta y siete en total de entre las que el jurado seleccionó seis finalistas finalmente se decantó por el proyecto denominado agravitas

una respeta cuidadosamente los valores históricos y las construcciones de mil novecientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta y dos mil uno a las que superpone una nueva e imponente galería dos extiende

tres vuelve a situar la entrada principal donde estuvo originalmente cuatro transforma la plaza arriaga en un gran atrio en torno a la fuente que puede ser usada de forma independiente de los horarios de funcionamiento del museo cinco

el aprovechamiento de la inercia térmica la captación de energía solar y la recogida de aguas de lluvia

oída la propuesta del jurado el patronato de la fundación acordó por unanimidad adjudicar el concurso

autores del proyecto agravitas con un presupuesto que asciende a los veinticinco millónes de euros proyectos finalistas estuvieron expuestos en el museo durante dos meses para su conocimiento público

en todo este tiempo tanto los representantes del gobierno como los de las otras instituciones vascas hemos estado comprometidos con la transparencia del proceso de adjudicación

con la solidez conceptual del proyecto y su adecuación a los procesos administrativos necesarios con que se ajustara en todos sus extremos a la normativa patrimonial y medioambiental y a la vez hemos buscado el mayor respaldo social posible para el proyecto éramos y somos conscientes de que los proyectos de nuevas infraestructuras son objetos

y por ello sometimos nuestro criterio y decisión al análisis de expertos independientes

la solvencia la seguridad normativa y la objetividad de nuestras decisiones una de las cuestiones a analizar era el nivel de protección que los edificios del museo tenían para ello solicitamos desde el servicio de patrimonio cultural a la catedrática de historia del arte de la universidad de salamanca maite paliza monduate

un informe sobre el devenir de los ciento veintiocho museos de españa entre ellos el de bilbao que en mil novecientos sesenta y dos fueron declarados monumento histórico artístico

con el propósito de asegurarles el estado la protección de sus colecciones el objeto del estudio era dar a conocer cuántos han sufrido ampliaciones e intervenciones de calado

la catedrática paliza concluye que un porcentaje muy elevado de aquellos edificios perdieron su protección

lo que nos lleva a deducir que el bien protegido son las colecciones más que los propios edificios que además no fueron dotados de ningún régimen especial de protección

entre ellos el de bilbao en mil novecientos sesenta y tres y mil novecientos noventa y siete

el informe cita otros once casos de modificaciones importantes o ampliaciones entre los que incluye las sucesivas ampliaciones del prado el museo nacional de escultura de valladolid el museo nacional del greco o el museo sorolla en madrid

ganadora el informe fue realizado y firmado por agustín azkarate

investigadores del grupo de investigación en patrimonio construido de la upv y director e investigador de la cátedra unesco respectivamente y por

el análisis concluye con una valoración positiva del proyecto arquitectónico avala

y a las ordenanzas urbanísticas y destaca el respeto a las construcciones anteriores

hemos sido en todo momento especialmente celosos y hemos actuado con la mayor seguridad en todas las fases de la tramitación del proyecto de ampliación así como en los procesos de información y exposición pública el mismo

la primera una decisión contra la concesión de la ampliación presentada ante la dirección de bellas artes del ministerio de cultura

un informe contrario al proyecto de ampliación hecho público por la comisión de monumentos y patrimonio histórico de la academia de bellas artes de san fernando ni el gobierno

ni el gobierno ni el museo hemos podido argumentar ni dar nuestra opinión sobre el proyecto que ha evaluado esta comisión ni se nos ha requerido documentación ni se nos ha dado la posibilidad de defender el proyecto

que no hay ningún motivo para suspender las decisiones que hasta el momento han adoptado las instituciones competentes por considerar que han sido correctamente adoptadas por tanto

dando los pasos precisos el museo ha remitido al ayuntamiento de bilbao el proyecto básico de la ampliación el pasado mes de enero y ha solicitado la correspondiente licencia

está previsto el cierre al público del edificio moderno el próximo mes de septiembre

y para finales de noviembre está prevista la adjudicación del proyecto

se estima que las obras de este proyecto de ampliación estarán finalizadas en julio de dos mil veintitrés eskerrik asko eskerrik asko

consejero por su información y efectivamente como yo también he dicho en la presentación de la

en relación con la posibilidad de la ampliación del museo de bellas artes de bilbao ante un proyecto cultural importante nosotros parlamentarios de este parlamento miembros de la comisión de cultura hemos estado allá hemos

ya lo conocíamos desde luego hace muchos años el museo pero hemos conocido institucionalmente también sus proyectos sus colecciones hemos hablado con su director

con la ampliación y con las necesidades de ampliación del museo

sobresaliente de una infraestructura cultural de primera como tenemos la suerte los vascos de tener en nuestro territorio pero también

elementos que no tienen que ver con la ampliación del proyecto sí o no sino que tienen que ver con el proyecto

o la puesta en duda de incumplir

dificultades al cumplimiento de esos artículos que yo he citado en la primera parte de mi intervención pues es cuando nos asaltan algunas dudas no sobre la necesidad no sobre el valor cultural sino sobre se está andando por el buen camino es decir porque estas cuestiones también pueden llevar a paralizaciones pueden llevar a impugnaciones de proyectos en definitiva es decir hay que y sobre todo desde los gobiernos y desde las instituciones que

todas las garantías nos da la sensación de que parece que hace falta un informe definitivo porque vamos a hablar de una guerra de informes pero sí de un debate una polémica jurídica

los que hicieron el informe que ha apoyado el gobierno y el ayuntamiento

un historiador y un arquitecto efectivamente

un informe que nos viene de un órgano tan especializado en la defensa

pone de manifiesto una serie de inconvenientes o sea que entendemos que es posible en un análisis sosegado frío de la situación que haga falta un informe definitivo objetivo independiente

de la ley de patrimonio cultural vasco usted ha hablado además

las actuaciones que conllevará la ampliación vale pues esas son las que sobre la mesa se ha puesto de manifiesto que puede que no se acomoden a la ley

esas intervenciones que hablan sobre la altura sobre la ocupación del espacio y del parque sobre la intervención sobre la plaza arriaga y que ahí está la clave de ese debate que también

en relación con el futuro de ese de la viabilidad jurídica

de ese museo otros han puesto de manifiesto también algunas cuestiones que tienen que ver con el jurado

esas son otras cuestiones lo importante en este momento es que tenemos que señalar que hay una sospecha de que

y en relación también con la otra polémica que hay sobre lo que usted ha mencionado colecciones o edificios en este momento todo el museo y el edificio

está protegido es un bien cultural y lo urbanístico o la reforma que le afecta está protegido por la ley de patrimonio cultural vasco

yo quiero simplemente para acabar recordar que hay un manifiesto ciudadano cívico en defensa del museo de bellas artes de bilbao

pone sobre la mesa el llamado proyecto agravitas el que lo consideran desafortunado y ponen una serie de de argumentos ellos dicen que vulnera las bases del concurso vulnera el plan general de ordenación dice que vulnera

habla de que constituye un proyecto distópico por resultar inoportuno hablan de la precipitada tramitación urbanística al margen del plan general es decir
al informe de san fernando se une una polémica ciudadana que yo creo que con un informe objetivo será bueno despejar eskerrik asko barrio jauna amaitu da denbora

zurea da hitza por decir verdades nadie debería ser condenado por eso quiero empezar mi intervención haciendo un apoyo explícito

la cultura es un bien esencial y por eso

no solo lo creo yo sino que el pasado octubre este parlamento aprobó por unanimidad poner en marcha nuevas ayudas

siempre ha sido muy importante pero hemos tomado conciencia de ello más si cabe durante la pandemia cómo hubiera sido nuestro confinamiento sin música sin teatro sin lecturas

pero la cultura la hacen trabajadores y trabajadoras y su crisis

su precariedad es constante la pandemia solo ha confirmado el desamparo social en el que está y su falta de derechos

qué planes tiene su departamento para poner en marcha las ayudas especiales que se aprobaron en la proposición no de ley que antes hemos mencionado

además de lo que usted ha dicho es para el ser humano sinónimo de aprendizaje entretenimiento convivencia y desarrollo del espíritu crítico nos ayuda a pensar

la cultura que consumimos necesita de personas y agentes que la creen la produzcan la muestren la difundan

y la conserven y estas personas y agentes especialmente las que desarrollan su actividad fuera del ámbito público necesitan el apoyo institucional más

el objetivo principal para este dos mil veintiuno segundo año de la era covid es trabajar para que la actividad cultural se mantenga también de forma presencial y para que teatros museos bibliotecas o archivos no interrumpan su actividad

euskadi es la única comunidad autónoma del estado español y de muchos de los países de nuestro entorno que ha mantenido desde el pasado uno de junio la actividad cultural presencial

intentarlo al menos que ha permitido a creadores y productores seguir creando ha permitido a los teatros y bibliotecas y museos abrir sus puertas y a muchos y muchas ciudadanas

para disfrutar de la cultura la segunda medida consistirá en asegurar que todas las convocatorias de ayudas dirigidas a los sectores de la cultura salgan adelante es más el martes pasado aprobamos en el consejo de gobierno las convocatorias para la producción de artes escénicas y la creación cultural el próximo martes

serán un total de diecisiete convocatorias para la promoción cultural

este año además tres de ellas serán nuevas en dos mil veintiuno por tanto habrá un total de veintitrés convocatorias con un importe total de trece coma tres millónes de euros en ayudas uno coma siete millónes más de euros que el año pasado dos mil veinte las convocatorias de ayudas son un apoyo fundamental en euskadi para el mantenimiento de la creación

al mismo tiempo hemos iniciado ya la tramitación de las subvenciones nominales que figuran en el presupuesto dos mil veintiuno de forma que su abono pueda acometerse adelantadamente

la movilidad como tercera medida el presupuesto de dos mil veintiuno contempla un fondo especial anticovid para la cultura hemos decidido en este inicio de año realizar una convocatoria especial de ayudas destinada a profesionales autónomos

y entidades profesionales del ámbito cultural que hayan sufrido descensos en sus ingresos en dos mil veinte con el objetivo de apoyar el mantenimiento de su actividad

consideramos que será una línea de ayudas importante para sostener las estructuras privadas de la cultura en dos mil veintiuno

hemos tenido presentes las consideraciones de los representantes

está siendo objeto de tramitación y de control jurídico y económico y daremos cuenta de ella en cuanto esté lista para su publicación en el boletín oficial eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor consejero sabía

un paquete de ayudas enormes y no dudo de su preocupación por la cultura pero imagino que coincidiremos que a estas alturas de la pandemia

ni llegan a tiempo por lo tanto no son efectivas mientras usted y yo hablamos de cultura los trabajadores siguen esperando a que les lleguen las ayudas que de verdad les solucionen el problema eso sí todos no esperan

altos cargos secretarías de altos cargos porque esos a ustedes los han nombrado bastante rapidito igual que rápidamente han ampliado el capital de e i te be

dos meses fueron los que tuvieron que esperar los trabajadores de la cultura hasta que ustedes pusieron en marcha las primeras ayudas las que por cierto solo llegaron

después tuvieron que esperar siete meses más para que se pusiera en marcha el circuito de artes en vivo

solo llegó a un porcentaje muy pequeño de los trabajadores del sector y los que además mejor protección social tenían ninguna de estas dos iniciativas resolvió ni la crisis ni la precariedad del ecosistema cultural señores sus ayudas no son efectivas y esto ya se lo he dicho antes

esperar en una crisis donde si tenemos algo claro es que la cultura es un bien imprescindible la cultura es absolutamente segura hasta cuándo van a tener que seguir esperando